desde elkarrekin podemos hemos impulsado esta iniciativa parlamentaria porque estamos preocupadas y por lo tanto entendemos que debemos ocuparnos

para todas las personas también para el colectivo de personas con diversidad funcional

nosotras apostamos por un modelo que busque también la rentabilidad social que esté ligado a la satisfacción de necesidades y al reparto de tareas socialmente sostenibles

que sea un medio para construir una sociedad más equitativa más justa y más sostenible para ello

qué nuevo modelo productivo limpio sin duda puede dar respuesta a estas necesidades y qué empleos son socialmente deseables además de cuánto y cómo se reparte ese empleo con criterios de justicia social y poniendo siempre la vida y a las personas

sin embargo estamos ante una realidad en la que el empleo tiene unas condiciones cada vez más precarias lejos de ser un factor de inclusión nos encontramos con temporalidad inseguridad aumento de los accidentes laborales incumplimiento de derechos y hasta persecución de la reivindicación por la defensa de los mismos

está siendo especialmente complicado para sectores de la población que histórica y estructuralmente el mercado laboral ha excluido y precarizado ninguna política es neutral

y recordamos las políticas de desarrollo económico tampoco lo son el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo por sí solos no son universales

muy al contrario pueden generar y profundizar brechas de desigualdad por todo ello el tiempo de definición de presupuestos de diseño y evaluación de estrategias de planes de proyectos de ley

e insistimos en la idea de justicia social y accesibilidad para todas en todas las políticas administrativas legislativas educativas económicas sanitarias culturales

hay que incorporar necesariamente la accesibilidad de la población para que las políticas sean realmente universales equitativas redistributivas no hay magia ni fenómenos naturales que lo resuelvan somos nosotras más bien ustedes desde el gobierno quienes deben diseñar y brindar políticas para toda la ciudadanía lo que requiere a nuestro juicio destinar recursos a políticas que corrijan las desigualdades de acceso que experimenta parte de la población hay que destapar y visibilizar las diferencias por edad por sexo por identidad de género territorio

y llevar adelante las medidas necesarias para que estas diferencias no se conviertan en desigualdades redoblamos esfuerzos para impulsar iniciativas que reviertan y contrarresten

apostamos con esta propuesta por el empleo ordinario también para las personas con diversidad funcional

recibimos y agradecemos enormemente los aportes que hoy traemos en forma de enmienda transaccional tanto de la confederación coordinadora de personas con discapacidad física elkartean

lan babestuaren elkartea sin duda ambos han enriquecido y mejorado nuestra propuesta inicial

en esta misma línea celebramos la buena disposición al diálogo e intercambio de todos los grupos y el acuerdo unánime al que vamos a llegar en esta cámara

acordamos que tanto las instituciones y empresas públicas como las privadas tienen mucho por hacer

porque a día de hoy no se está garantizando el acceso al derecho al empleo de todas las personas a un empleo ordinario al autoempleo al empleo público y eso lo sabemos porque por ejemplo en algunos datos que nos facilita elkartean nos comentan que solo el siete por ciento de las ayudas al empleo para personas con diversidad funcional son para fomentar el empleo ordinario

nos cuenta que la mayor parte de los contratos de personas con diversidad funcional son contratos temporales y que del veintiséis coma seis por ciento de personas que están empleadas el veinticuatro coma cuatro

son muy pocas las que acceden al empleo ordinario aunque es verdad que para afirmar esto con rotundidad necesitaríamos más y mejores datos pero eso irá viniendo nosotras entendemos sin quitar valor a las políticas impulsadas hasta el momento

a la generación de empleo protegido pero no han logrado crear en la misma medida empleo ordinario que brinde oportunidad a las personas discapacitadas y preparadas para asumirlo

consideramos que el modelo de empleo protegido es imprescindible y positivo y lo es como puente para el acceso al mercado laboral ordinario de algunas personas pero sin embargo parece haberse convertido en muchos casos en el lugar en el que muchas personas con diversidad funcional pasan toda su vida sin oportunidades de llegar a la otra orilla pese a su capacidad demostrada de sostener y desarrollar un empleo

accesible y fundamental y más que útil para algunas personas pero no indispensable para todas no necesario para todas porque por sí solo no es inclusivo y mucho menos si se convierte en un objetivo cuando lo que

las medidas de acción positiva como la cuota de reserva también son necesarias y por eso hoy venimos a reclamar su cumplimiento

pero de nuevo insuficientes por sí solas para transformar un mercado laboral bastante excluyente y esto lo décimos como un posicionamiento político desde la visión de la inclusión como algo que es responsabilidad de todas porque a todas nos afecta algo que es responsabilidad de todas porque en manos de todas está hacerla posible o alejarla y también lo décimos como una forma de reconocer a los agentes que trabajan por la inclusión de las personas con diversidad funcional

tienen de primera mano la experiencia del día a día de las personas con diversidad funcional y esa riqueza hay que aprovecharla creo que hoy hemos sabido hacerlo

pero son visiones complementarias y necesarias como complementario y necesario es que exista el empleo protegido para quienes no puedan acceder al ordinario o quienes precisen de un entrenamiento

es necesario y complementario como también lo es la visión del horizonte del empleo ordinario si no se corre el riesgo de perder el norte y que el empleo protegido se convierta en un nicho de trabajo que no incluye porque está al margen de lo habitual

si las personas con diversidad funcional no están presentes en nuestros empleos en el día a día de nuestras vidas el horizonte de la inclusión seguirá estando lejos para avanzar hoy aprobamos una proposición sobre la mano que nos tendió elkartean que nos comentaba que para que las personas con diversidad funcional ejerzan sus derechos sin duda se requiere

aprobamos estas nueve medidas la primera instar al gobierno a garantizar el acceso al empleo de las personas con diversidad funcional según la normativa la segunda instar al gobierno junto con agentes sociales e institucionales a realizar una reflexión profunda sobre este tema que hoy ponemos sobre la mesa la tercera

del cumplimiento del acceso a estas personas al empleo y a desarrollar medidas que avance en la inclusión social está claro que es una preocupación de todas las personas pero sobre todo

quinta un acceso igualitario a través de los servicios públicos concretamente de lanbide sexta

la igualdad de oportunidades a través de cuantas herramientas existan y se nos ocurran para mejorar la actual situación de las personas con diversidad funcional hacia marcos de vida y desarrollo universales pero universales de fondo séptima a impulsar el acceso de las personas en desempleo utilizando cuando sea necesario

como una herramienta que incremente habilidades y competencias como un paso fundamental para el acceso al empleo ordinario octava

impulsar de forma especialmente activa las primeras oportunidades también para las personas con diversidad funcional y novena exigir el cumplimiento de las cuotas de reserva establecidas en la ley como podemos ver hay reflexión hay propuestas concretas y hay materia prima suficiente para hacer la reflexión y reordenación profunda a la que nos invita esta proposición

además estas propuestas son consecuentes con el programa de elkarrekin podemos en el que ya apostábamos por el empleo ordinario como una vía real y potente para la inclusión social pensamos que en esta transacción están recogidas las principales ideas de nuestras propuestas pero además que se recogen las propuestas de representantes de la sociedad civil cuestión

consideramos además que esta proposición pone rumbo a políticas que prioricen el acceso de la población con diversidad funcional al empleo ordinario al autoempleo o al empleo público digno abierto accesible e inclusivo esperamos y solicitamos que este acuerdo sea una plataforma y que la voluntad política y los recursos

onartzen zaie y es en este escenario de reconocimiento de derechos y de dificultades y trabas para el desarrollo de los mismos donde se ubica la iniciativa que discutimos

en este parlamento cuando hablamos de la efectiva aplicación y cumplimiento de la reserva de la cuota de reserva prevista en el texto refundido de derechos de las personas con discapacidad una directriz que como nos señalan desde elkartean desde la asociación guipuzcoana para promover la inclusión de personas ciegas begiris

se incluyen casi sistemáticamente y ante la que urge incorporar elementos actuaciones medidas y compromisos que permitan que esta cuota sea realmente

y que contaban con un apoyo bastante amplio tanto político como social y leí un artículo en este sentido que

dos investigadoras y que preguntaban qué llevaba a los empresarios y a las empresarias a optar

las cuotas de reserva y hablaban de dos factores unos los evidentes

esas adecuaciones al puesto de trabajo y tal puedan ocasionarles más gastos y ese tipo de situaciones

y que radica en los temores de las posibles distorsiones que una persona con discapacidad puede introducir en el ambiente laboral ya que como persona singular y diferente que es algunas personas piensan que podría alterar los comportamientos o relaciones que se dan entre compañeras y compañeros estamos hablando

y con este tipo de situaciones pero estamos hablando también de valores de normas sociales de actitudes individuales y de imaginarios colectivos esto nos demuestra que todavía hay mucho que hacer en el terreno de la igualdad de oportunidades

y en la generación de entornos laborales inclusivos abiertos y accesibles y remarca la importancia de cambiar el contenido de las normas

y hay que cambiarlas para poder garantizar su efectividad y su exigibilidad y también es necesario incidir normas sociales y favorables que favorezcan actitudes individuales positivas hacia el trabajo normalizado de las personas con

a las personas con discapacidad con el empleo protegido

necesitamos mentes abiertas para explorar nuevas posibilidades reales inertzia horiek ere puskatu beharra dago

legebiltzarkideok arratsalde on guztioi antes de empezar

felicitarnos por el acuerdo al que hemos sido capaces

un acuerdo que bajo mi punto de vista mejora sustancialmente la propuesta inicial un acuerdo que desde luego no hubiera sido posible sin la flexibilidad el entendimiento el dialogo y sobre todo también sin las aportaciones que desde diferentes colectivos se nos ha hecho llegar

vuelve a poner de manifiesto la capacidad de entendimiento que tiene esta cámara y especialmente en aquellas materias relativas al empleo creo que este no es el primer acuerdo de este tipo al que se llega en esta materia y espero y deseo sin duda alguna que no sea el último lo que estamos haciendo hoy de alguna manera es reeditar renovar el compromiso que se adquirió desde esta misma cámara

que va a lo nuclear un compromiso que tiene un recorrido desde el concepto básico de lo que debe de ser la integración la igualdad de oportunidades hasta las medidas concretas que se deben adoptar desde las diferentes para que las políticas que pongamos en práctica no solo sean efectivas sino que también sean permeables una permeabilidad que debe de calar mucho más allá de lo público que no se debe de quedar únicamente en lo público que deben provocar un compromiso

de las empresas privadas de cierto tamaño porque no habrá una inclusión social plena hasta que la conciencia global de toda la sociedad no asimile de caminar hacia una igualdad plena porque sin ese compromiso público y privado se estaría aplicando una restricción de sus derechos fundamentales

individual se estaría obstaculizando su desarrollo y eso señorías sería una negación absoluta del derecho a hacernos más iguales por eso no hemos querido ser conformistas por eso no hemos querido limitarnos a respaldar la propuesta de origen por eso hemos querido

en la solicitud del cumplimiento de la legalidad exclusivamente en el apartado referido a la reserva del porcentaje de puestos de trabajo para las personas con diversidad funcional tanto en la administración como en la empresa privada los socialistas

con realizar un balance de las situación actual para en una segunda fase instar a la elevación de los cupos de reserva tal y como propone podemos en su propuesta

porque sabemos positivamente del resultado negativo de ese balance por eso hemos querido adelantarnos ahorrar tiempo

desde el minuto uno y para ello nuestra compañera rocío de frutos

ya registró una proposición no de ley el pasado seis de febrero en la que exigimos una revisión al alza de la cuota de reserva además

de hasta un total de diez que van en consonancia con la enmienda a la totalidad que presentamos aquí en su momento y con la transacción a la que llegamos el pasado mes de junio en este mismo parlamento por eso hoy los socialistas vascos volvemos

siendo vigilantes y escrupulosamente exigentes en cuanto al cumplimiento de todo lo establecido en el texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y aprobado mediante real decreto legislativo uno barra dos mil trece un real decreto

dejaba sin efectos a través de la disposición derogatoria única de dicho texto la ley trece barra mil novecientos ochenta y dos de integración social de las personas con discapacidad

señores de podemos siguen dando por vigente la parte expositiva de su proposición no de ley cuando hace tiempo que fue derogada

activado un dialogo social con todas las asociaciones y colectivos relacionados

porque son interlocutores imprescindibles en la consecución de una reflexión constante para la obtención de una mejora continua en la reordenación y puesta en marcha

de la situación de ese colectivo en cuanto a su empleabilidad y el fomento

que sea celoso en cuanto al establecimiento de mecanismos para realizar un seguimiento constante al nivel de cumplimiento de los objetivos de acceso gradual de los trabajadores y trabajadoras

a lo que desde el grupo parlamentario socialista añadimos no solo en cuanto a esos objetivos concretos sino al seguimiento relativo al cumplimiento de toda

cuarto haciendo nuestra la propuesta anunciada por la consejera socialista de trabajo la señora maría jesús san josé de aumentar el número de efectivos destinados a realizar

en cuanto al objetivo de garantizar plenamente el cumplimiento de la normativa laboral en el tema que hoy nos ocupa quinto implicando activamente al tejido empresarial vasco

la sensibilización y el contacto con los agentes sociales que trabajan en este ámbito potenciando su papel a través de lanbide y a través también

acuerdos de colaboración en labores de intermediación entre esos agentes sociales y la empresa privada una intermediación que si me lo permiten es inevitablemente necesaria es imprescindible y que debe tener como objeto la promoción del pleno acceso al empleo ordinario entre las personas con diversidad funcional

de que no existirá una plena integración sin un acceso normalizado ordinario y en condiciones de igualdad para esas personas tanto en lo público como en lo privado

a ese mercado laboral aumentando los recursos para los centros especiales de empleo centros fundamentales imprescindibles también en la obtención de la capacitación del aumento de la estabilidad de la competencia y la capacidad

no pueden acceder a un puesto de trabajo ordinario en condiciones

del acceso a un primer puesto de trabajo como garantía de obtención de una formación práctica necesaria e imprescindible también como base

ordinario estable y de calidad y aquí es imprescindible poner en valor y poner en práctica medidas en las que se impliquen

vascas pero como decía anteriormente los socialistas no solo seremos condescendientes no solo participaremos activamente desde nuestro papel en el gobierno y también desde nuestro papel como grupo representativo de una parte de la sociedad en esta cámara

y continuaremos trabajando como lo hemos hecho hasta la fecha bien desde el papel de gobierno bien desde el papel de la oposición en cualquiera de las instituciones en las que estemos

en el cumplimiento de los derechos de este colectivo como vía para su plena integración y la obtención de unas condiciones de vida dignas porque solo así haremos posible un futuro en el que todos y todas podamos vivir de verdad en plena igualdad eskerrik asko

ni mucho menos pero es cierta y clara la preocupación de este parlamento por los temas sociales

y muestra de ello es el acuerdo adoptado en junio por unanimidad de los grupos parlamentarios presentes en relación a la empleabilidad de las personas con discapacidad o diversidad funcional

propuestas contraofertas nos ha costado un poco pero al final

de todos los grupos respecto al asunto que nos ocupa porque como porque la transacción alcanzada hoy tiene como base

con un poco más de literatura y concreción pero en el fondo el acuerdo es el mismo si bien es cierto que entonces hablábamos de empleo en general y ahora nos centramos más en la empleabilidad de este colectivo en empleo ordinario

es cierto que se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por elkartean y también

también es cierto que no es la primera vez que se les escucha en este parlamento y estoy segura que se continuará haciendo y que esta no va a ser la misma ni muchísimo menos todas las medidas recogidas en la enmienda transaccional

además en la mayoría de los puntos acordados se busca la empleabilidad de estas personas con discapacidad en el empleo ordinario nos parece una reivindicación más que razonable se debe de impulsar desde las instituciones y también desde la sociedad

la contratación de las personas con discapacidad en el empleo ordinario a fin de que puedan conseguir una vida independiente y digna

que dentro del colectivo de personas con discapacidad funcional o con discapacidad existen muchas variables circunstancias y situaciones que hacen imposible o por no decir que algo es imposible

en el empleo ordinario por eso nos parece también importante poner en valor la gran labor que hacen y han venido haciendo los centros especiales de empleo creemos que su trabajo sigue siendo imprescindible y por eso hemos insistido en que se recoja en la enmienda transaccional y lo hemos hecho a través de mención expresa

evidentemente esto no quiere decir que no hayamos de velar por intentar integrar al máximo de personas con discapacidad en el empleo ordinario ni muchísimo menos

dejar fuera del mercado laboral precisamente a las personas con diversidad funcional que mayores dificultades tienen para el acceso de empleo y que lo consiguen

deba de servir de sustituto al empleo ordinario pasaré a detenerme en alguno de los puntos de la enmienda transaccional que me parece importante reseñar pero muy en pinceladas puesto que ya han sido mencionados por más de un representante

interesante hacer una reflexión con todos los agentes e instituciones implicados sobre el empleo de las personas con discapacidad funcional bien en el empleo ordinario entendiendo como tal tanto el autoempleo como el empleo público

se está hablando de empleo ordinario o en el empleo protegido y o centros especiales de empleo

puntos tercero y cuarto de la enmienda transaccional nos parece también vital hacer un seguimiento sobre el grado de cumplimiento del acceso de este colectivo al empleo ordinario y de intensificar la labor de la inspección de trabajo a fin de avanzar en la inclusión laboral de las personas con discapacidad en cuanto a la labor de la inspección de trabajo también hemos tratado y tendido en este parlamento y en innumerables ocasiones y sabiendo que es una competencia del estado etcétera se ha hecho el esfuerzo y al final de la legislatura pasada también quedó acordado que se iba a implementar la plantilla

y concienciación de la sociedad en general y del mundo empresarial en particular en quinto

pueden recibir orientación laboral bien directamente por los y las profesionales del servicio vasco de empleo o por las entidades colaboradoras de dicho servicio siendo ellas las personas con discapacidad quienes deciden libremente cómo recibir la orientación necesaria y esto lo queríamos plasmar también y lo hemos plasmado en la transaccional porque parecía que

plenamente reflejada y que quedara claro beraz amaitzeko bakarrik esan poztu egiten garela aho batez

gracias señora presidenta señor lehendakari señora consejera señorías buenas tardes a todos yo creo que está todo dicho en este punto y es difícil expresarlo mejor

que han plasmado sus iniciativas en este acuerdo por el esfuerzo que se ha hecho para que sea aprobado por

una unanimidad que ya existió en junio del año pasado en la comisión cuando en líneas muy similares ya se expresó la voluntad de esta cámara pero este acuerdo tiene algo más tiene una impronta que lo mejora si cabe respecto de aquella decisión es sencillamente que ahora se recogen también las aportaciones que desde elkartean se nos han hecho llegar a todos los grupos

las fuerzas políticas de la cámara están de acuerdo en el mismo objetivo y que además ese objetivo recoge las opiniones y las querencias de las asociaciones que representan a este sector tan sensible y tan

creo que el acuerdo nos permite precisamente instar al gobierno al cumplimiento de una normativa que es bastante adecuada no tenemos no necesitamos exhortar

uno barra dos mil trece recoge todos los derechos en condiciones que creo que todos los miembros de esta cámara aplauden en condiciones de acceso

para las personas que tienen diversidad funcional pero ya la propia exposición de motivos de esa norma

la inclusión de las personas con capacidades diferentes en el mercado laboral de una manera obligatoria y porque la ley lo dice sino que tiene que ir más lejos

a un empleo ordinario y esa exposición de motivos lo que nos llama la atención o a lo que exhorta

sino en pensar en lo que aportan las personas que tienen capacidades diferentes en el puesto de trabajo es decir una sociedad que ya no mira exclusivamente el cumplimiento de unas mínimas cuotas de empleabilidad

lo que esas personas con capacidad diferente pueden aportar a las empresas no exclusivamente respetar el libre derecho que tienen ellos a optar a cualquier puesto de trabajo sino que pensemos en qué es

a las empresas y a los puestos de trabajo en los que ellos desarrollan ese derecho ese marco normativo que recoge todas las líneas europeas o las declaraciones

refundido de la ley de contratos del sector público que exige a las administraciones públicas a que no puedan contratar en las mismas condiciones que no se puede contratar con empresas que no estén al día con sus cuotas de la seguridad social o no estén al día

de impuestos con las correspondientes haciendas forales o la agencia estatal tributaria tampoco quienes no demuestren quienes no justifiquen que no cumplen estos requisitos de cuotas de empleabilidad no podrán contratar con las administraciones públicas y puesto que tenemos un marco legislativo estamos todos conforme lo que tenemos que hacer es exhortar al gobierno precisamente a que vigile y que en la medida de sus posibilidades también lo cumpla que lo cumpla en esta parte última que he comentado de la ley de contratos del sector público que se vigile escrupulosamente exigimos al gobierno que se vigile y se controle escrupulosamente el cumplimiento de esas cuotas de empleabilidad en las empresas de más de cincuenta

a que en cumplimiento de la normativa desde el departamento de trabajo bien multiplicando el número de inspectores y sobre todo multiplicando las inspecciones e incluyendo este punto en sus líneas de actuaciones en sus planes sectoriales anuales

las empresas privadas sí que cumplen estos requisitos y allá donde no se cumpla que es mucho el trabajo que queda por hacer que se castigue con todo el peso de la ley y finalmente exhortamos también al gobierno a través de para que se fomente la formación de las personas con capacidades diferentes para que puedan acceder no solamente al empleo protegido también dentro de los

a puestos de trabajo ordinarios puesto que ese es el espíritu que recoge la ley y es el espíritu que recoge el acuerdo de esta cámara muchas gracias eskerrik asko

bai gauza txiki bat señora arregi no he querido decir y si lo he dicho mil disculpas que elkarrekin haya venido aquí a inventar la rueda ni de lejos

lo reitero ahora la valía y la importancia que nosotras consideramos que tiene el empleo protegido y si no se ha entendido así en mi discurso quiereo que quede claro

que la transacción es muy mejorable a lo que presentábamos en origen

que todas hemos asumido aquí que no se están cumpliendo

pensábamos que tenía que ver con eso seguiremos aprendiendo seguiremos mejorando y seguiremos trayendo desde luego las iniciativas en esta y en otras materias que consideremos

les sorprende porque igual no ha venido nunca no lo sé son muchos años y mucho recorrido sin más agradecer de nuevo a todos los grupos el esfuerzo

gobierno a cumplir con su labor y asumir el liderazgo que le toca en una materia tan importante mila esker eskerrik asko

ruiz de arbulo su apoyo he hablado de los grupos

mi agradecimiento desde luego que evidentemente podrán venir muchísimos temas señora guanche faltaba más temas que no se hayan tratado de eso se trata de traer cuestiones que incluso no se hayan tratado y señora kortajarena

que lo que no entiendo es que después de haber llegado hace tan solo unos meses a un acuerdo de transacción que era tremendamente más rico más completo que la enmienda

peguen un repaso a lo que se aprobó a lo que ustedes firmaron la pasada legislatura

lo que hemos conseguido entre todos entre hoy no sí sí pero la pasada legislatura ustedes firmaron un acuerdo de transacción con todos nosotros que era infinitamente mejor

y desde luego que sí para entre todos poder enriquecer en la medida de lo posible todos los acuerdos
que podamos traer a esta cámara gracias eskerrik asko andueza jauna

buenas tardes gracias señora presidenta señorías cada uno de nosotros cada habitante de euskadi

al año en euskadi casi un ocho por ciento de los alimentos que compramos se tiran a la basura sin ni siquiera cocinarlos por ejemplo en cataluña

y treinta y cinco kilos de despilfarro por persona y año se estima que son alrededor de ochenta y ocho millónes de toneladas de residuos alimentarios en europa lo que corresponde al veinte por ciento de la comida que se produce en términos económicos son ciento cuarenta y tres millónes de euros al año

de ce o dos el seis por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de la unión europea los datos los miremos como los miremos son

agraria inicial hasta el consumo

en los países de ingresos bajos la mayoría de los alimentos se pierden en la fase que va desde la producción al procesamiento por el contrario en los países de ingresos altos y medios las pérdidas en desperdicios son generados fundamentalmente por hábitos de consumo

analizadas distintas experiencias se considera fundamental acometer el problema de las pérdidas de desperdicio en un concepto global de cadena alimentaria teniendo en cuenta los distintos o cada uno de las fases de producción

también en la distribución mayoristas minoristas la fase de consumo en el hogar en la restauración y derivados y los canales cortos de comercialización

los residuos alimentarios se han convertido en objeto clave de las políticas europeas de los últimos años

herramientas que nos ayuden a tener una visión más cercana sobre cómo cuantificar los residuos en cada etapa cómo

recoger los avances correspondientes en informes que nos vayan

a gestionar estas pérdidas y este desperdicio la unión europea se propone reducir el cincuenta por ciento del desperdicio de alimentos para el año dos mil veinte hace cuatro años presentamos en esta cámara una iniciativa llamando la atención sobre esta realidad la necesidad de actuar con el objetivo de reducir los residuos alimentarios objetivo clave en las políticas europeas de los últimos años hace escasamente un mes se presentaba en bilbao

que agrupa a cincuenta y seis empresas universidades y centros de investigación alimentaria de trece países europeos y alguno fuera

y se propone diseñar estrategias para conseguir reducir a la mitad los desperdicios que se producen en el sector agroalimentario además de reducir un cuarenta por ciento la utilización del agua en los procesos productivos y también aminorar un treinta por ciento para dos mil treinta

invernadero que en estos procesos de elaboración se producen y emitimos a la atmósfera está claro señorías

debe tender hacia una economía eficiente en el uso de los recursos

y los consumidores también debemos tomar conciencia de la importancia y la relevancia de ser organizados a la hora de comprar productos perecederos

en los hogares en la restauración y similares como decía antes es importante evaluar la realidad de este problema también en euskadi porque podemos hacer mucho y debemos hacerlo nuestros hábitos comportamientos y los avances que hemos conseguido en estos últimos años para como decía limitar esta pérdida de desperdicios de alimentos

evaluar conocer tenerlos en cuenta y con esos resultados proponer herramientas que nos ayuden a rebajar esos porcentajes de pérdida que tenemos

citado antes como decía hace cuatro años presentamos una pnl en esta cámara hubo un acuerdo mayoritario

instábamos al gobierno para que hiciese acciones y actuase para reducir el volumen de desperdicio de alimentos en la comunidad autónoma

al final de legislatura pedimos una comparecencia de la señora consejera para que nos diga qué se había hecho no tuvo lugar legislatura terminó y lo que instamos en este proyecto en esta proposición no de ley es a que el parlamento inste al gobierno vasco a que en el plazo de dos meses presente un informe de evaluación de las acciones desarrolladas para limitar las pérdidas y desperdicios de alimentos en el país vasco especificando qué administraciones y agentes sectoriales intervienen en cada acción

avances conseguidos tanto en investigación para la reducción de desperdicios alimentarios tanto en el impulso de cadenas cortas de distribución alimentarias más sostenibles

solidaria para el aprovechamiento de excedentes alimentarios en colaboración con los bancos de alimentos vascos sí que es verdad que hay cosas que se están haciendo tenemos

en alimentos perecederos por lo tanto sí que algo se está haciendo pero es necesario hacer mucho más y sí es importante

en tanto en cuanto se avanzan herramientas nosotros también podemos hacer cosas en el día a día principalmente en la pedagogía que hay que trasladar a la ciudadanía

diarios podemos contribuir de una manera muy importante a la reducción de ese porcentaje de desperdicios de alimentos por lo tanto señorías esta es la iniciativa que traemos a esta cámara

el desperdicio de alimentos es una de las consecuencias indeseadas de nuestra sociedad de consumo quizás no es la más notoria pero sin duda es la más sangrante

en los campos se destruyen cosechas solo para mantener alto los precios nuestros barcos pesqueros de altura

simplemente porque no cumplen con los estándares de forma o tamaño que demandan los mercados

se retiran alimentos en buen estado simplemente porque se acercan a su fecha de consumo preferente en los restaurantes se cocinan menús que luego nadie consume en las cadenas de comida rápida se sirven raciones desmesuradas

su fecha de caducidad esto sucede a diario también en euskadi aquí cada día se desperdician mil toneladas de alimentos en buen estado que podrían haber sido

pero en este oscuro panorama hay una buena noticia una muy buena noticia podemos y debemos cambiar esta situación

la diferencia que hay entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente a través de la educación continua

para que la comida no se acumule estérilmente en los frigoríficos

tenemos la oportunidad de concienciar a las nuevas generaciones de explicarles que el planeta produce ahora mismo el doble de los alimentos que necesita y que solucionar el problema del hambre

sino de cómo los repartimos pero también está en nuestras manos en lugares como este parlamento

paguen un precio justo por los productos agrícolas pesqueros y ganaderos en lugar de utilizar su poder financiero para especular con los alimentos arruinando a quienes los producen y podemos en último término apoyar desde el gobierno un modo de producir y consumir que facilite que los alimentos de aquí

y que podamos abastecer nuestras escuelas hospitales y residencias con alimentos producidos aquí sanos

porque conviene no olvidar un matiz importante euskadi importa el noventa y cinco por ciento de los alimentos que consume y en esto consiste la soberanía alimentaria está en nuestras manos elegir si desarrollamos un sector agrícola pesquero y ganadero robusto y sostenible o si seguimos dejando a nuestras baserritarras y a nuestros arrantzales

la economía también tiene relación con otro aspecto fundamental en este debate que por desgracia suele pasar desapercibido el de la sostenibilidad de nuestro sistema alimentario

todos los alimentos necesitan agua energía y suelo fértil que son tres recursos naturales cada vez más escasos producir un tomate exige trece litros de agua y cada caloría de proteína de ternera que llega a nuestro plato ha precisado cuarenta calorías

por eso cuando digo que importamos el noventa y cinco por ciento de nuestros alimentos en euskadi entenderán ahora que con ellos estamos importando el agua la energía y el suelo fértil que ahora mismo nos estamos ahorrando aquí pero que algún día podríamos necesitar

también se está despilfarrando el agua la energía y el suelo fértil

su propia soberanía alimentaria por todas estas razones

presentada por el partido popular cuyo contenido no hace sino recordar al gobierno los deberes que ha estado incumpliendo durante estos últimos años en una materia tan sensible como esta sin embargo lamentamos que a la hora de citar a los diferentes agentes involucrados en la puesta en marcha de un sistema de aprovechamiento de los excedentes alimentarios el grupo proponente tan solo haya tenido en cuenta a los bancos de alimentos

no está causado solo por una gestión ineficiente no es ante todo y sobre todo la consecuencia de un modelo de consumo injusto

que consigan que esos excedentes no se produzcan y esto en última instancia nos apela al papel de los bancos de alimentos

pero la solución al hambre y a la pobreza si me lo permiten es que los bancos de alimentos no tengan razón de ser que no tengan razón de ser porque las personas

tengan garantizada la satisfacción de sus necesidades básicas mínimas para que comer a diario no sea un acto de caridad sino de justicia social a día de hoy el despilfarro de alimentos es la imagen del derroche y del despilfarro de quienes tienen de sobra frente a la necesidad de quienes no alcanzan a tener lo suficiente

es por lo que nuestro grupo se abstendrá finalmente en la votación de esta iniciativa mila esker

han pasado cuatro años como decía desde que se aprobara el diseño de una estrategia encaminada a limitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos hoy el partido popular de nuevo nos lo trae

demostrando que no solo no se han dado los pasos suficiente para acabar con la situación

en un tema como este donde no solo deberíamos llegar a un acuerdo por unanimidad sino que

y porque el fracaso que supone la no gestión de estos alimentos que no desperdicios es alarmante

estamos en una situación como ya hemos oído hoy aquí donde el consumo también el consumo sin sentido es una forma de vida donde el individualismo se antepone a la solidaridad

una sociedad con desigualdades y que debemos afrontarlas además tal y cómo son y cómo las vivimos gure betebeharra irakurketa serio bat egitea da

podríamos derivar o concentrar el tema intentando buscar cómo paliar las consecuencias sin ir al inicio de la cadena pero sería hacernos trampas al solitario

y que hoy tenemos la gestión de los alimentos desde luego que es responsabilidad de todos y todas está claro y que está en nuestra mano gestionar esto de la mejor manera posible ya lo hemos escuchado

no nos olvidemos de nada sirve traer de nuevo una proposición no de ley si no reconocemos que el problema no está únicamente en investigar los pasos que se han dado sino cómo aprovechar los excedentes alimentarios sin ir al fondo de toda la cadena los tres puntales principales de la cadena alimentaria tienen su responsabilidad de qué

cómo se distribuyen y qué se consume y desde luego una reflexión yo diría que en alto es más que necesaria en el inicio de esta cadena está la parte productora el sector primario como decía nuestro compañero

que dirigen tanto las producciones las cantidades como la forma de producción y que recibe más quien más tierra tiene políticas agrarias que poco están ayudando para convertir

que pueda producir para comer y que pueda sobrevivir sin necesidad de las ayudas que lo condicionan una política agraria que sustenta a este sector absolutamente dependiente un sector atado de pies y manos y que no podría sobrevivir sin estas ayudas que llegan de europa

ni de sus propias decisiones una política agraria que impulsa la cantidad frente a la calidad la gran producción frente a las pequeñas labranzas que impulsa la desigualdad al fin al cabo

en el sector primario en todo el mundo son consecuencia directas de las mal llamadas yo diría políticas agracias además quien lo diría cuando ahora hay libertad de cuotas de producción

hay personas y cada vez más personas muriéndose de hambre y nosotros nosotras hablando de qué hacer con lo que sobra algo estamos haciendo mal mal

la apuesta desde eh bildu desde luego es la soberanía alimentaria pero como eje de país no una soberanía alimentaria que queda en la teoría no una soberanía alimentaria que garantice

que marque una coherencia entre la oferta y la demanda cosa que estamos viendo que no que no se cumple el libre mercado la liberalización de cuotas que estamos viviendo desde luego no garantiza en que todas las personas puedan comer

estamos hablando de comer un libre mercado que no ha ayudado a instalarse a personas jóvenes en los pueblos que no ayuda a producir por encima de costes

y que ni siquiera ayuda a garantizar que la población tenga para comer así que por eso estamos hoy aquí no voy a entrar en datos porque creo que todos y todas los hemos visto pero bueno

sí necesario digo peligroso por la importancia que tiene en toda esta cadena y porque condiciona absolutamente las reglas del juego de todos y de todas una gran distribución que en general antepone intereses económicos buscando beneficios sin mirar a los lados es una parte de la cadena crucial desde luego es necesaria

hoy en día la gran distribución tiene un objetivo empresarial que es comprar barato para vender caro

día a día vemos como el pequeño comercio va desapareciendo de las ciudades y las grandes firmas pues dirigen el mercado a su verdadero antojo así que nos queda por último hacer

como actor necesario porque tiene la última palabra tan sencillo kontsumitzea ez da dirua gastatzea bakarrik zentzuz kontsumitu aukera pertsonal bat da

gure esku dago gauzak aldatzea el primer objetivo como sociedad debe ser evitar crear residuos restos pérdidas desperdicios a partir de ahí

a un consumo justo sería la mejor forma de evitar excedentes alimentarios

lo que nos parecía que podía ser que encima creíamos que aportaba pero parece ser que bueno pues que no va a ser fácil llegar a un acuerdo por un lado solicitamos el informe de evaluación que debería de estar hecho desde hace varios años ya por lo que veo

en ese informe desde luego hay que especificar qué administraciones y qué agentes implicados han intervenido y tienen que intervenir a partir de ahora vemos también importante

cortas de comercialización estamos absolutamente de acuerdo en eso lo acabo de decir

para aprovechar los excedentes pero una mesa efectiva una mesa que incluiría agentes entidades sociales integrados

y desde la producción hasta la gestión de los desperdicios voy a dar un dato que nos hace colocarnos en la realidad y realmente colocarnos fuera de esta cámara que es la realidad

o en el famoso oasis vasco no parece que entremos y cabemos todas hay muchas personas que están fuera y a las que hay que dar respuestas urgentes porque además es que no tienen tiempo porque están pasando hambre es tan sencillo

por esto entendemos la necesidad de poner en marcha una campaña de comunicación fuerte con dos objetivos y además unos objetivos muy concretos

relativos al sistema vasco de protección social prestigiándolo y fortaleciéndolo como no puede ser de otra manera

y por otro lado explicar a la ciudadanía los derechos que les corresponde como ciudadanía

donde se hable de alimentos y de ganancias es responsabilidad de todas las administraciones desde la de más arriba como esta hasta más abajo

de instituciones ni de la voluntad de la distribución ni de la voluntad de las personas ni siquiera

poder elegir alimentos sanos de calidad pero no los restos que los demás no quieren o los restos que sobran creo que eso no es elegir si los bancos de alimentos tienen una labor fundamental si las distintas entidades sociales y agentes son necesarias es porque esta sociedad vuelve a fracasar una vez más

somos personas con trabajo muchas veces con un trabajo precario no solo son personas inmigrantes son

no pueden llegar a final de mes dejémonos de discursos yo lo que pido en esta cámara no solamente en este caso sino en otros más

y dar la responsabilidad y poner el foco en quien de verdad tiene la responsabilidad no convirtiendo los restos de comida en limosnas que llegarán a las personas en función de lo que otras no quieran

muchas gracias presidenta los datos sobre desperdicios alimentarios son preocupantes estamos hablando de que en nuestro país se tiran todas las semanas a la basura veinticinco coma cinco millónes de kilos de alimentos mientras hay cada vez más familias que no pueden comprar alimentos y personas rebuscando en los contenedores de basura los residuos alimentarios se producen de toda la cadena la producción la distribución en tiendas en restaurantes

hogares la lucha contra la pobreza pasa también por conductas colectivas que impidan el injusto derroche de la comida falta también sensibilización pública sobre las consecuencias sociales y medioambientales que esta actitud conlleva hay otras causas que pueden tener que ver como el etiquetado de los productos alimentarios y la confusión que este etiquetado genera en los consumidores

a desechar alimentos innecesariamente hasta un tercio de la comida que se desperdicia en los hogares es derivada del etiquetado de los alimentos hay productos en que los fabricantes utilizan criterios diferentes

de las partes comestibles de los alimentos producidos para el consumo humano se pierden o lo que representa más de mil trescientos millónes de toneladas de alimentos cada año van a parar a la basura en todo el mundo

de hambre las pérdidas de alimentos en los países industrializados son

en desarrollo con la diferencia de que en los países en desarrollo más del cuarenta por ciento de las pérdidas de alimentos se producen en las etapas de almacenamiento y procesamiento mientras que en los países industrializados más del cuarenta por ciento de las pérdidas de alimentos se produce en la venta minorista y en el consumo

considera que la disminución de las pérdidas y el desperdicio de alimentos al incrementar la eficacia global de la cadena alimentaria podría

así como a mejorar el acceso a los alimentos y a la adaptación de los sistemas alimentarios al cambio climático

a cabo en europa se podría evitar el sesenta por ciento del despilfarro de los alimentos en los hogares eso supondría un ahorro

quinientos sesenta y cinco euros por hogar y en el ahorro medioambiental equivaldría a la retirada de uno de cada cinco vehículos en circulación el informe del comité económico y social de la unión europea de dos mil trece hablaba

analizar desde una perspectiva global ya se ha dicho aquí desde la cosecha hasta el consumo en toda la cadena

adoptó un objetivo de reducir a la mitad los residuos alimentarios por habitante a nivel de los consumidores y de los minoristas así como de reducir las pérdidas de alimentos hasta el dos mil treinta y tres la unión europea y sus estados miembros se han comprometido a alcanzar dicho objetivo en el plan de acción de la unión europea se señala que los residuos alimentarios constituye una creciente preocupación en europa

desde la necesidad de facilitar la donación de alimentos que aún son comestibles pero que por razones logísticas o de comercialización no pueden ser comercializados no existe sin embargo ningún método fiable ni armonizado para medir los residuos alimentarios en la unión europea eso es un problema y es importante que en la unión europea se elabore una metodología común para medir los residuos alimentarios

sin comprometer la seguridad de los mismos y es importante que las administraciones públicas contribuyan a fomentar comportamientos responsables que permitan a los consumidores

que sean desperdiciados en el parlamento vasco

ya se debatió una propuesta similar a la de hoy y se aprobó

una iniciativa del grupo popular y se aprobó con el apoyo del grupo nacionalista vasco y el grupo socialista y los populares vascos

desarrollaran acciones comunes que contribuyeran a modificar actitudes y procedimientos dentro del sistema de gestión que permita limitar esas pérdidas y desperdicios de alimentos y se daban distintas acciones a abordar

a estos temas por otro lado hubo otra iniciativa el cinco de mayo del dos mil dieciséis iniciativa también a propuesta del grupo

dos puntos que se presentaban aquella vez en esa iniciativa y se instaba al gobierno vasco a crear una red solidaria para aprovechar estos excedentes estos son los antecedentes un poco a la propuesta

que se ha planteado hoy aquí debemos implicar a todos los agentes que forman parte de la cadena alimentaria es cierto que se han implementado varios intentos para reducir los desperdicios tanto a nivel nacional como a nivel autonómico pero es cierto

que hay que seguir creando una mayor conciencia y que queda todavía

por hacer por eso a nivel nacional nuestro grupo parlamentario el grupo socialista acaba de presentar en el congreso de los diputados una proposición no de ley el nueve de marzo de este año con el fin

de pedir al gobierno que se siente y que coordine a todos los agentes de la cadena de alimentos y comercialización

llegue a los bancos de alimentos así como otra serie de iniciativa como proponer por ejemplo incentivos fiscales

en la duración de los productos diversificación del tamaño de envases campañas informativas e incentivos de reutilización para productos sobrantes ha pasado tiempo estoy de acuerdo con la proponente desde que

era muy similar a la que luego se debatió aquí en el año dos mil dieciséis como he señalado

que era importante dado el tiempo transcurrido realizar esa evaluación que planteaba

la iniciativa original y no presentamos enmienda por tanto a esta iniciativa y que esa se realice en breve porque ya establece un plazo de dos meses nosotros consideramos que eso era importante y por tanto como he dicho no presentamos ninguna enmienda

y nosotros mi grupo el grupo socialista apoyará la iniciativa inicial presentada
por el grupo popular nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea

ahalmena falta zaizkigulako y no voy a hablar hoy ni de soberanía alimentaria ni

donde se solicita que el gobierno presente una serie de informes o informe yo

de lo otro la legislatura es larga estoy seguro que vamos a poder debatir y contrastar ideas vaya por delante que vamos a apoyar la propuesta pero también

hacerles saber señora lópez de ocariz que vamos a señalar las carencias de la misma

me reitero en la de la propuesta y su escasa originalidad que uno podía esforzarse y ser innovador por otro lado se está refiriendo la propuesta suya a una iniciativa aprobada en un parlamento del pasado dirigido a un gobierno del pasado y por mucho

somos los mismos cerebros y algunas y algunos miembros del gobierno

ya son diferentes en este caso un parlamento solicita a un gobierno efectuar una serie de acciones y un parlamento posterior exige a un posterior gobierno datos que demuestren que aquello que pidieron nuestros antecesores a los ancestros del gobierno

tendríamos que empezar por debatir una solicitud al nuevo gobierno para que actúe en determinado sentido y después solicitarle datos para confirmar

por otro lado la propuesta señora lópez de ocariz no deja de ser un método de matar moscas a cañonazos el elenco el abanico

propuestas que puede ofrecer el reglamento de este parlamento para presentar esto puede ser desde una pregunta por escrito pregunta oral una comparecencia en comisión de la consejera

ha decidido venir a un pleno y que gastemos una hora u hora y pico en debatir el tema pues bien lo vamos a aprovechar todos para debatir sobre el tema

pero bueno pasaremos de todas estas formalidades y en cualquier caso le pediremos al gobierno que nos informe como buenamente pueda del tema lo que en ningún caso en ningún caso debería dar por finalizado el debate de un asunto como este

y sobre todo mucho más relevante que lo que le pedimos al gobierno que nos informe y ya que lo ha tramitado como una pnl ante el foro de un pleno parlamentario voy a aprovechar para reiterar la importancia de este asunto aunque no voy a repetir

estos días justo hace tres años pues está en las actas de la cámara sí creo

algunos datos porque es importante que a la ciudadanía le lleguen datos contundentes

de alimentos desperdiciados en el mundo en los cinco continentes en los cinco

millónes de kilos al año el cinco por ciento en la distribución el catorce por ciento en restauración

y el cuarenta y dos por ciento en los hogares en el hogar en euskadi desperdiciamos

medio kilo de alimento por persona y semana en total cincuenta y cinco millónes de kilos de alimento al año en euskadi entre todas y todos los vascos más en concreto desperdiciamos el diecinueve por ciento de pan y cereales el diecisiete por ciento de la fruta y el trece por ciento de la leche y yogures que hemos comprado en conclusión desperdiciamos mucho

y social sobre la materia y es verdad que el gobierno y las administraciones algo pueden ayudar en ir avanzando sobre el tema eso es verdad pero no tengamos

volcar toda la responsabilidad de lo que pasa en los poderes públicos ni pensemos que lo solucionemos o no por lo que nos informa el gobierno qué ha hecho o ha dejado de hacer

en el cuarenta y dos por ciento de lo que desperdiciamos en euskadi es una responsabilidad quizá movida por un mundo que nos empuja a lo excesivo también es verdad pero el acto del consumo

se puede investigar para el aprovechamiento de los sobrantes alimentarios o se puede impulsar la cadena corta de provisión de alimentos pero al final los agricultores los grandes y los pequeños dejan en el campo más de lo que deben dejar las industrias las grandes y las pequeñas

y nosotros que somos los que más desperdiciamos compramos más de lo que somos capaces de consumir por cierto por mucho que le demos vueltas al tema

démosle recursos para que lo obtenga o apoyemos a los bancos de alimentos

que es de lo que hoy estamos hablando lo que desperdiciamos es lo que no podemos comer porque hemos compramos más de lo que somos capaces de digerir

o se nos queda duro por ancianidad y no parece que lo podrido o lo duro a eso se le dé un uso solidario

estamos hablando fundamentalmente de desperdiciar de una sociedad exagerada que consume más de lo es capaz de procesar lo cual

supone un gravísimo problema ambiental lo que desperdiciamos ha consumido agua y recursos naturales sin ningún objetivo

hay un ejemplo reino unido hizo un estudio en el que

la conclusión en eliminación de emisiones de ce o dos a la atmosfera era equivalente a quitar un coche de cada cuatro de la circulación en todo el reino unido eso nos tiene que evidenciar que el problema medioambiental que tenemos es muy serio en conclusión

hay que promover cadenas cortas de alimentos hay que intentar aprovechar de alguna manera aparte del alimento

si cada una y uno de nosotros continuamos por la senda del acopio excesivo poco vamos a poder hacer

más que con estudios que también se podría hacer si cada uno de nosotros toma conciencia real del tema lo que me lleva a un recuerdo de la infancia

en una mesa e intentando dejar algún recurso alimenticio encima de la mesa

no me dejaba desperdiciar jamás el pan y siempre me decía que tenía que pensar en el hambre que se pasaba en el mundo y tenía razón aquel pan que yo quería desperdiciar había consumido energía y recursos utilizables

y también voy a recordar una cosa del anterior debate porque sé que gustó a algunos más y a otros menos pero podríamos volver a la práctica ancestral

la de no tirar nada de lo que cada día sobra guardarlo y consumirlo como un gran festín el sábado de canelón o de croqueta porque todo lo albardado gana gana mucho y si no miren por ahí fuera y verán cómo el albarde funciona y triunfa

más se podría hacer si este parlamento trabajaba directamente para sensibilizar a la sociedad que nos eligió sobre la importancia de reducción de sobrantes alimentarios y sobre lo importante que es cada una y cada uno de los consumidores en su casa sobre este tema el cuarenta y dos por ciento

ni podemos continuar nosotras y nosotros como parlamentarios tenemos mucho que decir somos representantes de la ciudadanía y este foro tiene altavoces mediáticos que nos permiten llegar a las cuatro esquinas de este país para terminar y sin que nada mejor se me ocurra de momento podíamos empezar por promover

que contenga una frase de chesterton que decía el derroche no es poético porque es destructor el ahorro es poético porque es creador y así si además de enseñar a digerir

les invitamos a todas y a todos a ser poéticos y con esa poesía

aprobemos los presupuestos por unanimidad muchas gracias eskerrik asko

sí señora presidenta si me lo permite desde el escaño efectivamente creo que todos coincidimos en lo importante en que tenemos unos datos

del residuo que generamos en todos los procesos de la cadena alimentaria hasta que llega al consumo y también en el consumo luego hay quien aporta

quien habla de si la producción tiene que ser de una filosofía o no la soberanía alimentaria temas en los que no vamos a entrar y que no

y cómo reducimos ese volumen porque se puede reducir

esa es la obligación de la administración por eso está esta iniciativa en esta cámara y señor tellería tampoco voy a entrar en sus provocaciones que es lo que a usted le encanta pero usted sabe que al final de la legislatura en abril del dos mil dieciséis

para que explique el alcance y el avance de las medidas en este aspecto en cumplimiento de la iniciativa que se aprobó en esta cámara y dicha comparecencia

y en esa etapa lo que quiero es evaluar en este momento y creo

qué no ha hecho la administración qué está haciendo la industria privada que también está haciendo cosas

otras iniciativas otras actividades y otras actuaciones desde la parte administrativa y desde la parte privada pero la administración debe ser la impulsora de muchos aspectos por lo tanto señor tellería usted a sus ocurrencias nosotros a trabajar por los problemas que se generan en esta sociedad esa es nuestra impronta y el objeto de nuestra iniciativa

señor tellería me defrauda lo siento me defrauda porque aun apoyando la proposición no de ley que presenta el partido popular que

pues yo solo como mínimo me queda pedirle que hubiesen hecho una proposición mejor o que hubiesen apoyado la nuestra porque yo creo que iba enriquecida si es por ese lado

no me gusta oírle hablar la verdad me parece un tema mucho más importante sé que son las cinco y veinte de la tarde que tenemos ganas de marcharnos que

pero creo que estamos hablando de personas que no llegan a final de mes que no pueden comer superproducciones

si no me lo va a contar a mí y desde luego a qué precios y en qué fundamento

y en lo que acabamos riéndonos sinceramente yo no he venido aquí para esto eskerrik asko eskerrik asko mesedez

brevemente desde el escaño simplemente pues reiterar que por parte de mi grupo

y ya hemos dado en la primera intervención las explicaciones de

si no fuese por ustedes qué sería de euskadi desde luego menos mal vamos a ver yo he apoyado

porque me parecía razonable y me parece bien que el gobierno venga y lo explique insistiré en que es una proposición que es extemporánea que se tenía que haber hecho en la legislatura pasada que es otra legislatura y que por tanto

traficado desde la mesa como un formato de solicitud de información punto pero bueno

su enmienda tiene un punto entre ellos que es un corta pega de una de la semana pasada de tema social

de comunicación en relación con el sistema vasco de protección social y yo le he dicho

con la protección social no tiene nada que ver y desde luego si usted cree que yo me

explicar que la responsabilidad mayor en estos momentos de la pérdida de alimentos es de cada uno y cada una de nosotros que perdemos el cuarenta y dos por ciento

tiene que ver con nuestro sistema de consumo de compra vale entonces eso es lo que he intentado explicar y lo he intentado hacer con ironía y didácticamente hablando de croquetas y canelones que era lo que hacíamos en mi casa oiga era una broma lo que hacíamos en mi casa o qué porque usted ha venido aquí ahora y ha dicho no voy a hablar mucho porque tenemos mucha prisa para irnos yo no tengo prisa para irnos

estaría hablando de ese tema todo lo que sea necesario eso es frivolizar

a intentar explicar un tema y lo intento hacer didácticamente con los recursos que yo tengo

y volveré a insistir la pérdida de alimentos el cuarenta y dos por ciento es en el consumo individual

porque el consumo es compulsivo en esta sociedad y hay que entrar en ese esquema evidentemente también es consumo excesivo y agotamiento de recursos

con una camiseta distinta que no va a tener luego otro uso en toda la vida eso ha gastado recursos de todos
para que lo luzcamos durante cinco minutos muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

inadmisibles y carentes de sentido ataques como los producidos en los campus universitarios de leioa y álava

bi el uso de la violencia deslegitima cualquier reivindicación el diálogo y la palabra constituyen la base para una convivencia pacífica y democrática la universidad

todo tipo de ideas pero incidentes como estos vulneran el fundamento de la misma hiru